legebiltzarkideok egun on guztioi los socialistas defendemos el contrato programa pero no este y espero aportar razones suficientes para que la mayoría de este parlamento

nosotros los socialistas consideramos el contrato programa una herramienta esencial mediante la cual

establecen los objetivos y condiciones generales en las que se ha de basar la labor de e i te be en este marco de negociación e i te be propone sus actuaciones y obtiene por parte del gobierno

uno de los objetivos es conseguir una financiación transparente sostenible y eficiente creemos que esta fórmula debe basarse en la transparencia

este es uno de los fundamentos por los que nuestro grupo proponemos una reforma integral de la ley del ente en la que entre otras cosas se establezca

sea aprobado por este parlamento de manera que sea este legislativo

con el seguimiento de los compromisos adquiridos y con los sistemas de evaluación y valoración del cumplimiento de los objetivos pactados otra razón para implicar al parlamento en este asunto es que es a él a quien le corresponde aprobar la distribución de los recursos

hasta la firma del contrato programa dos mil dieciséis dos mil diecinueve el vigente era el firmado en dos mil doce

cumpliendo con la voluntad de los socialistas respecto al contrato programa aquel fue un acuerdo

y a los requisitos exigidos por el gobierno aquella firma constituyó un ejercicio de responsabilidad

a futuros gobiernos el gobierno socialista dejó sus deberes hechos

no ha trabajado al ritmo que se requería para dotar a e i te be de un elemento de gestión tan importante como el contrato programa su actuación en este asunto es fiel reflejo

tuvimos que ser la oposición y más concretamente los socialistas

dar las soluciones y plasmarlas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma

le ha correspondido el gobierno menos diligente más de tres años le ha costado al gobierno firmar este contrato programa algo que se corresponde con la ínfima actividad legislatura que ha desarrollado ha remitido veinticuatro proyectos de ley de los cuales escasamente la mitad han sido aprobados

en el mismo periodo el gobierno de patxi lópez consiguió que se aprobaran veintidós leyes los socialistas

hemos estado preocupados durante toda la legislatura por la ausencia de un contrato programa actualizado por ello preguntamos en más de una ocasión sobre la situación del mismo

por el seguimiento del vigente como por los avances en la elaboración del nuevo ninguna respuesta concluyente todo eran meras generalidades ni siquiera se respondía a preguntas tan concretas como el número de reuniones de la comisión de seguimiento

el nuevo como digo todo eran balones fuera cuando correspondía a la dirección de e i te be se respondía e i te be tiene contacto regular con el departamento de educación

vinculados con el ente y sus sociedades cuando le preguntábamos al gobierno

con la dirección general de e i te be han sido numerosas las reuniones que se han mantenido

que tenían tanto el gobierno como dirección sobre el asunto la respuesta nos la ha dado el tribunal vasco de cuentas

dice textualmente para el ejercicio dos mil trece no se ha firmado ningún contrato programa ni se ha reunido la comisión de seguimiento del mismo habiéndose prorrogado

es decir gobierno y dirección de e i te be no ha trabajado con seriedad en este asunto es al final de la legislatura durante el que sin duda va a ser último ejercicio de la misma

que para mayor asombro le adjudican un alcance temporal que prácticamente abarca la siguiente legislatura no han respondido a lo que era su obligación en la actual

sigan con su modelo un modelo que por otra parte se ha mostrado caduco fracaso en cuanto a relaciones laborales niveles de audiencia gestión empresarial relación con el entramado de producción audiovisual en

pretenden consolidar un modelo que agoniza y lo hacen intentando condicionar los presupuestos futuros algo fuera del alcance tanto de la actual dirección como del actual gobierno

donde se deberán elegir representantes en función del modelo del país de cada uno también del modelo de e i te be

sabiendo todo esto sabiendo que seguir la deriva que lleva e i te be es condenarla la explicación que tiene este contrato no es más que una formar parte de la campaña electoral en la que también se incluyen

de última hora sin futuro a esos planes que se nos anuncian para dos mil veinte

fía todo según la celebración de autobombo de la semana pasada esto no es un contrato programa una apariencia la nada porque tras tres años sin hacer nada

como se hizo en dos mil doce dado que les quedan meses contados de legislatura o simplemente haber prorrogado el de dos mil doce como se hizo en dos mil trece dos mil catorce y dos mil quince pero han elegido otra cosa

nace de la comparecencia de hace un mes en la que la directora y la consejera explicaban complacidas este contrato y como ya dije entonces no ha habido ninguna reflexión sobre la radio televisión que necesitan los vascos no el pnv analizando los canales plantilla necesaria organización empresarial tipo de relación etcétera que diera satisfacción a la necesidad del servicio público después con un diagnóstico profesional y político

nada de eso se ha hecho no existe ninguna reflexión ni análisis previos y nos encontramos con unos compromisos por las dos partes

ni a las posibilidades presupuestarias que a su vez tiene el gobierno vasco

de la dirección de e i te be y del gobierno que ya nos avanzan con este contrato programa que lo que quieren para la próxima legislatura es más de lo mismo pero con más recursos aparte de esas consideraciones generales carencias y faltas de concreción importantes en el articulado

carencias que nosotros vemos en ese articulado

aun siendo uno de los retos más importantes no se concreta ni inversiones ni plazos para implementarla de manera general todos los indicadores para la evaluación se concretan en horas de emisión a nuestros entender el número de horas

sino en todo caso de mayor coste el tema del deporte aparecen varios apartados pero creo que

como ha quedado patente en el debate del primer punto de esta sección y como ha expuesto mi compañera rosa fresno ni siquiera se han tenido en cuenta los criterios de igualdad

aparecen en el documento dos novedades que a nuestro juicio son preocupantes porque pueden suponer costes suplementarios cuáles son la facultad de financiar

de filiales y la posibilidad de endeudamiento señoras y señores del gobierno y del pnv

es cierto que no han tenido en cuenta la opinión y resoluciones de la mayoría de este parlamento pero no van a negar que toda la oposición se ha manifestado en contra de su modelo de gestión

llegamos a pedir la dimisión de la directora de e i te be que por unas u otras razones todos estamos en desacuerdo con la línea editorial que desarrolla tuvieron ustedes

haber contado con nuestra opinión haber permitido el análisis y la crítica constructiva haber hecho el esfuerzo para sumar a pesar de que obviamente no es un requisito legal estén seguros que de haber contado con la opinión de todos el resultado hubiera sido más satisfactorio y ajustado a los tiempos creo haber aportado razones más que suficientes para que corrijan su error retiren el contrato programa y elaboren uno nuevo ajustado a lo que resta de mandato en esta decisión y como me queda tiempo suficiente y con permiso de la presidenta quiero ver con esto un recuerdo para aquellos hombres y mujeres

hicieron posible el periodo de libertad y democracia que supuso la

gracias presidenta buenas tardes con esta iniciativa que defendemos semejante muy semejante a la iniciativa del grupo socialista

instar al gobierno vasco a dejar sin efecto el contrato programa de e i te be firmado el pasado día veinticinco de febrero es decir instamos queremos que este parlamento inste al gobierno vasco a retirar este contrato programa

y a la consejera de educación política lingüística y cultura del gobierno vasco consideramos que este contrato programa que el gobierno vasco y la dirección general de e i te be suscribieron el pasado día veinticinco de febrero

retirado nosotros también defendemos la fórmula del contrato programa fórmula que nace para vincular al gobierno vasco que aporta la financiación a e i te be ente que se compromete a realizar una serie de servicios y a llevarlos a cabo de una forma determinada este contrato programa recientemente firmado como digo debe ser retirado y explico sucintamente brevemente creo que también claramente

avalar esta propuesta primera razón este parlamento vasco el cinco de febrero de dos mil quince pidió la dimisión de la actual

un hecho creo lo suficientemente relevante como para considerar no solo que esta directora general de e i te be lleva desde entonces ocupando un cargo que no debería sino que además mucho menos puede pretender decidir el futuro de e i te be o condicionarlo

cuatro años no tiene legitimidad ni para seguir en el cargo mucho menos para pretender condicionar el futuro de e i te be durante los próximos

perfectamente segunda razón este parlamento acordó el pasado día siete de mayo la creación de una comisión especial que sentara las bases de la reforma

comisión que debería haberse creado antes del treinta y uno de diciembre del año pasado y que debería haber presentado un dictamen con las conclusiones antes de finalizar el primer trimestre

del ente público no tiene sentido que este contrato programa

debe realizar ya que todavía no los ha realizado y sobre todo al propio propósito y al deseo y la voluntad

por parte de todos los grupos de esta cámara de impulsar una reforma de e i te be porque consideran los grupos consideramos los grupos que el modelo actual está

el deseo claramente expresado por parte de estos grupos de que hay que reformar profundamente el modelo de e i te be una mayoría de grupos así lo defendemos

del gobierno vasco y de la actual dirección de e i te be de perpetuarlo tercera razón esta legislatura está a punto de finalizar se convocarán pronto elecciones autonómicas y los ciudadanos elegirán un nuevo parlamento por lo que en nuestra opinión no tiene sentido que el contrato programa se firme y se acuerde unos pocos meses antes de que todo esto no tiene ningún sentido por lo tanto esta sería la tercera razón lo que pretende el gobierno es en fin dejar todo atado y bien atado

franquista trata de pretender que todo siga igual y condicionar el futuro de e i te be unido a ese contrato programa no tiene ningún sentido cuando

unas semanas o incluso unos días para que esta legislatura

cuarta razón el contrato programa como ya se ha dicho se ha presentado tarde y además no ha sido negociado ni acordado ni tiene el apoyo de esta cámara ni de los partido políticos aquí presentes por lo tanto no hay consenso esta es también una razón de peso para argumentar y pedir al gobierno que retire este contrato programa el gobierno tuvo tiempo de presentarlo mucho antes no lo hizo en su momento y presentarlo a falta de unas

no tiene tampoco ningún sentido y quinta razón y última este contrato programa pretende perpetuar el mismo modelo agotado y fracasado

en lugar de impulsar su reforma estas son las cinco razones que nosotros planteamos a la consideración de los grupos para que finalmente se vote a favor de esta transaccional

grupo socialista y upyd ojalá pudiera aprobarse esta iniciativa pero tristemente conocemos habilidades del partido nacionalista vasco para enel último momento conseguir el apoyo de alguno de los grupos lo hemos visto también hoy por la mañana y quizás también hoy cuente por la tarde con la ayuda de eh bildu para que esta iniciativa no salga adelante veremos qué es lo que ocurre estamos muy preocupados por ello pero

y las razones expuestas también creo que este contrato programa debe ser

buenas tardes a todos gracias señora presidenta pues efectivamente como se ha dicho aquí el veinticuatro de marzo se presentó en la comisión de control de e i te be el contrato programa firmado entre el gobierno vasco y el ente público euskal irrati telebista

cosas muy diferentes aquí de las que dijo en esa comisión

es decir cuya vigencia va a durar hasta el dos mil diecinueve y en el que por parte del gobierno vasco

importantes es decir que la vigencia y los efectos de este contrato como aquí se han dicho este contrato programa van a ir más allá

a otra dirección y a otro ejecutivo este grupo ya dijo que probablemente el principal objetivo de este contrato programa

las contraprestaciones de cada una de las partes firmantes sino sobre todo blindar la financiación de e i te be

y la verdad es que resulta chocante hubiera ya resultado chocante que se blindase esa financiación sin tener la mayoría suficiente para hacerlo en ese primer año de legislatura pero resulta todavía más chocante que se haga a pocos meses de las elecciones se nos dijo que no se había podido hacer antes

eran inciertas pareciera por lo tanto por lo que se dijo en esa comisión que ya se pueden echar las campanas al vuelo y que ya la situación económica de euskadi

sin embargo tenemos también como después del consejo vasco de finanzas del mes de febrero el propio consejero de economía y hacienda el señor gatzagaetxebarria comentó que había que ser muy prudentes y mostrar cautela hasta que se aclarase el confuso panorama de la economía internacional

económicas sean tan ciertas y parece que existen otras cuestiones que debieran exigir el compromiso por parte del gobierno vasco

y sin embargo no se hace porque eso sí que se deja al albur de cómo vaya y cómo evolucione la economía sin embargo la financiación de e i te be no

pasar en un futuro en esa comisión se puso de manifiesto como efectivamente es así que ese contrato programa constituye la definición de las relaciones entre el gobierno vasco el ente público e i te be se nos explicó el contenido del mismo y contenido que se corresponde como decía con la financiación que va a aportar el gobierno vasco y por otra parte con los compromisos asumidos con e i te be desde aquí quiero decir que este grupo sí está de acuerdo con que exista un contrato programa

los contenidos de ese contrato programa expuesto ahí de los principios y de las bases de actuación también podemos estar de acuerdo pero no solo creo que el grupo popular sino también el resto de los grupos pero la cuestión no es poner una serie de principios y compromisos en un papel

para que luego se queden en eso en buenos propósitos porque el camino se demuestra andando y la verdad es que si algo ha demostrado esta dirección y algo ha demostrado e i te be a lo largo de estos años es que los compromisos están recogidos en el contrato programa pueden estar y no sé

en el presente no se han cumplido ni en los años anteriores tampoco no se ha cumplido lo relativo a la objetividad veracidad e imparcialidad en las informaciones

hay objetivos evidentes evidentes como que la televisión pública y la radio pública tienen que tener carácter de servicio público

y objetiva que tienen que conseguir determinadas audiencias y tampoco se han conseguido ninguno de esos objetivos

las audiencias estamos en los peores índices de audiencia que nunca haya tenido el ente público

mejor y tampoco se ha conseguido que sea como he dicho antes un servicio público que responda a los principios de imparcialidad pluralidad y veracidad no ha sido así claramente e i te be se ha utilizado como instrumento al servicio de un gobierno

de una determinada ideología política por eso como dije en comisión y quiero reiterar hoy aquí más allá de los equipos directivos más allá

lo fundamental es un replanteamiento del concepto de e i te be como servicio público

un replanteamiento del concepto que tiene este gobierno y la dirección de e i te be no se trata de quién lo dirige que también sino de cómo se dirige y el cómo se dirige ya digo que es al servicio del gobierno y del partido que lo sustenta y eso es lo que hay que cambiar

y cómo debe funcionar mientras que no se modifique esto

ni existirá publicidad ni desde luego será un servicio público por eso creo y lo dije y lo quiero a reiterar ahora esta dirección y este gobierno no tienen credibilidad

de imparcialidad de independencia de respeto al pluralismo político de índices razonables de audiencia de gestión de personal como decía claro que estamos de acuerdo en muchos compromisos y en muchos principios contenidos en el contrato programa y que esos principios y compromisos sean asumidos por e i te be como servicio público pero repito es que esos no son el dar cumplimiento a esos principios no son

para e i te be y para el gobierno vasco a la hora de firmar y de presentar este contrato programa el objetivo de este contrato programa el que de verdad pesa es el contenido en las páginas treinta y cuatro y treinta y cinco que como decía al principio no es otro que garantizar la financiación de e i te be de aportar aparte de lo que se aporta en este año un millón ciento dieciséis mil seiscientos sesenta y cuatro coma ochocientos cuarenta y cinco millónes de euros en el dos mil diecisiete

euros en dos mil diecinueve y además como decía es fundamental cómo se cumple el contrato programa cuál va a ser la e i te be

un análisis del modelo de e i te be que queremos un análisis de la plantilla que queremos

que queremos todo ello debiera de haberse hecho antes de presentarse ese contrato programa porque aquí lo que se ha hecho es poner el carro delante de los bueyes lo que se ha hecho es comprometer al gobierno que saldrá después de las próximas elecciones

en una situación de inseguridad económica financiera por mucho que se dijese lo contrario en la comisión y a una serie de principios y a un modelo de e i te be

pero las inversiones para realizarlas tienen que demostrar que son productivas

deja serias dudas comprometer a una futura dirección de e i te be cuyo modelo como decía puede ser distinto o al menos

modelo tiene claros síntomas de agotamiento como se ha dicho hoy aquí un modelo que está haciendo que nuestra televisión cada día vaya perdiendo más audiencia más calidad

en este tiempo de gestión de la actual dirección la televisión pública vasca no se guía por criterios profesionales como ya se ha dicho en otras ocasiones esta gestión está dañando la imagen de e i te be se haya dañado la imagen de los propios profesionales cuya valía se ve empañada

todo el ente al servicio de unos criterios políticos muy concretos y lo están haciendo como hemos dicho siempre con el dinero de todos los vascos y ahora quieren comprometer ese dinero de todos los vascos

al margen de cualquier criterio profesional y periodístico objetivo y lo peor es que no tienen ninguna intención de cambiar ese rumbo y pretenden imponer ese rumbo al siguiente ejecutivo y a la siguiente dirección de e i te be quieren seguir comprometiendo a futuro nada menos que hasta el dos mil diecinueve el dinero de todos los vascos en un modelo que esta fracasado por ello nosotros solicitábamos que se retirase el contrato programa que hasta que se

del plan estratégico finalmente hemos firmado una enmienda

maneiro y al señor unzalu en el que más o menos venimos a pedir lo mismo que se retire este contrato programa porque desde luego creo que no es ni el momento

lehen konpromisoa kalitatezko informazio bermatzea garantizar una información de calidad

ela denuncia al ararteko la política informativa de e i te be gaur gaurkoa

twitter kontu ofizialean eaj pnv pide que la emakumeen bira

eaj pnv ni el grupo popular ni el socialista

manipulación con todas las de la ley eta horrekin aurkitzen gara egunetik

su capacidad de engatusar y de embaucar al señor maneiro y a la señora

y desde luego mucho menos raposear vamos a ver la enmienda que ustedes han presentado es prácticamente el texto del partido socialista y siento decirle

sino que es profundamente ridícula es profundamente ridícula vamos a ver usted lo que está pidiendo es que se elimine el actual contrato programa

otro para cinco meses a lo sumo para la duración de la actual legislatura cinco meses es lo que viene aquí es lo que usted propone pero usted se piensa que esto es serio o sea que si a este parlamento hoy

mañana lo que iba a hacer es denunciar ese acuerdo y poner en marcha uno por cinco meses con qué criterios con qué cálculos con qué ratios

esto no es serio esta propuesta es profundamente decepcionante y fuera de lugar no tiene ningún tipo de sentido un contrato programa para cinco años

efectivamente como le decía antes ya fueron los que le quitaron la característica plurianual al contrato programa de e i te be y le puedo asegurar

no es ni ha sido nada fácil en el marco de las relaciones entre el departamento de cultura y la dirección de e i te be que son unas relaciones evidentemente de exigencia de compromiso donde unos exigen a otros no ha sido nada fácil

del contrato programa y el contrato programa afortunadamente en estos momentos es plurianual y el contrato programa se ocupa de lo que se ocupa tampoco se le puede atribuir

una cierta perplejidad porque creo que en los argumentos que ha puesto

ha coincidido plenamente con los del partido popular con los de upyd y con los míos con los del partido socialista ha hablado de que no es el momento

que no es lógico hacerlo al final de una legislatura aunque está de acuerdo con

que no ha habido consenso y que este contrato programa habiéndose evidenciado a través de toda la legislatura

y con el departamento con e i te be y que saquen esto diríamos a uña de caballo o por lo menos a golpe de decreto como así puede ser

señor urruzuno creo que usted ha dado los argumentos para decirle al gobierno que retire este programa ha dado los mismos argumentos que hemos dado nosotros por lo tanto yo le insto le apremio a que efectivamente

en relación o en concordancia con sus exposiciones vote la enmienda transaccional que hemos firmado nosotros con

cuando nosotros planteamos esta comisión especial porque fue una iniciativa del grupo socialistas vascos allí por el mes de mayo de dos mil quince creíamos que era una herramienta importante fundamental para hacer

profundo de qué tendría que ser e i te be a futuro porque señor urruzuno e i te be cambia las circunstancias del entramado audiovisual cambia cada año prácticamente y por lo tanto esa reflexión

que en aquella sesión de siete de mayo de dos mil quince además a instancia de su grupo se solicitó también

contratara que el parlamento encargara a la upv la elaboración de una metodología para seguir los debates

de esta comisión especial para seguir esos debates esos análisis pertinentes qué es lo que ocurre que ese documento se ha presentado al parlamento en febrero de este año y además como usted conoce igual que todos lo conocemos

en ese documento exhaustivo tengo que decirlo en ese documento en esa metodología exhaustiva de análisis

realmente puede ser una buena herramienta para llegar a esa conclusión que yo creo que todos queremos por lo menos la oposición en esta cámara queremos que e i te be se adapte

dice ese documento que hace falta año y medio para su desarrollo por lo tanto

que no tenía mucho sentido comenzar estos trabajos de la comisión especial para que

teniendo en cuenta además que previamente este mismo trabajo esta misma metodología de la upv lo que solicita es una serie de estudios sociológicos de encuestas a la población para ver y para sustentar el análisis posterior

tendría un horizonte muy superior incluso a esta legislatura por eso

para su debate en este pleno una proposición no de ley para que el gobierno comience con aquellos aspectos que tienen que ver con la opinión de la ciudadanía con los estudios sociológicos para que esté

dicho documento o puedan estar preparados y los trabajos de esta

su momento se acuerde tengan unos puntos de apoyo más importantes

tendría que contestarle al señor uribe etxebarria pero antes de nada quiero decir que nosotros el grupo socialista vamos a mantener el nuevo modelo

la secretaria general candidata a lehendakari idoia mendia conmigo mismo sobre lo que queremos que sea el nuevo modelo de e i te be nosotros tenemos una propuesta que la vamos a poner sobre la mesa siempre y que es una propuesta que realmente creo que puede dar lugar a

una reflexión importante y cambiar el modelo que por otra parte

exageraciones verbales que usted dice de todas formas lo que usted

es que había muy poca empatía entre el departamento de cultura y la dirección porque ha dicho que le ha costado no sé cuánto tiempo

el concepto de plurianualidad no es algo que nosotros reneguemos de él lo que pasa

la plurianulidad no se puede utilizar a beneficio de parte

utilizar la plurianualidad para comprometer a gobiernos futuros esa es la cuestión y eso es lo que ustedes han hecho y

tener que trabajar entre el departamento y la dirección de e i te be muy poca empatía entre un departamento y un ente que depende del mismo

sí gracias presidenta como se habrán fijado el portavoz del grupo nacionalistas vascos en esta ocasión no he hablado yo de la gestión

de e i te be por parte de la actual dirección del ente o por parte del partido nacionalista vasco no he dicho yo las cosas que he solido decir cuando hemos hablado de e i te be creo que ha tenido oportunidad de comprobarlo no he repetido

el partido nacionalista vasco y el gobierno vasco utilizan e i te be en beneficio propio

de hoy y creo que me he centrado en tratar de explicar cuales son en nuestra opinión las cinco razones fundamentales

no tiene ningún sentido presentar un contrato programa cinco meses antes de que se convoquen unas elecciones autonómicas y además de esa razón he dado otras y ciertamente señor uribe etxebarria no

planteado ningún contra argumento a ninguna de estas razones por lo tanto no doy tanta importancia yo al contenido concreto de este contrato programa

durante los últimos años creo que no es el debate de hoy y además he señalado también que apoyamos la fórmula del contrato programa

por qué no tiene sentido presentar un contrato programa un día como el veinticinco de febrero y he explicado cada una de esas razones por cierto el señor unzalu

que nosotros habíamos presentado también una iniciativa y que se están debatiendo

la misma idea mire las razones son estas se las repito hace un año este parlamento pidió la dimisión de la actual directora general de e i te be hace un año este parlamento dijo que no podía seguir en su puesto por eso teniendo en cuenta esa circunstancia no solamente nos parece ilegítimo que esta persona siga en su puesto sino incluso que nos parece mucho peor que esta misma persona trate de alargar

el actual modelo de e i te be para los próximos cuatro años esta es una razón usted quizás tiene argumentos para contrarrestarla no digo que no pero le pido que lo haga

nos pueda convencer a algunos de los grupos le he dado otra razón que creo que es de peso y es que este parlamento acordó la creación de una comisión especial que pusiera las bases del modelo que queremos para e i te be es decir este parlamento se expresó claramente

adecuarlo a los nuevos tiempos por esto tampoco tiene ningún sentido que unos meses después sin que esta comisión se haya constituido y mucho menos haya elaborado ningún dictamen se nos presente por parte del gobierno vasco por parte de e i te be un contrato programa que digamos olvida esta cuestión esencial la voluntad de este parlamento

tercera razón cuando se presenta este contrato programa apenas faltan unos pocos meses para la finalización

puede cambiar bastante lo más razonable es que se espere unos meses para la presentación

aisladas porque todas ellas suman y

que plantea upyd además este contrato programa como ya se ha dicho por parte de algún otrogrupo no ha sido ni negociado ni acordado y finalmente este contrato programa aproximándonos aunque sea someramente al contenido del mismo lo cierto es que trata de perpetuar un modelo y agotado por lo tanto no se trata tanto de decidir hoy el nuevo modelo para e i te be ni de acordar hoy el contrato programa no no pretendemos tanto es imposible

este contrato programa pero ya digo incluso más allá del propio contenido e incluso más allá de la gestión llevada a cabo por parte de e i te be durante los últimos meses estas son por lo tanto las razones señor

en su segundo turno yo le pido de verdad por el bien de la política que si tiene usted

nos la explique pero que no hable de otras cosas estas son las razones que upyd plantea para pedir la retirada de este contrato programa la fórmula del contrato programa en general la apoyamos pero este contrato programa planteado en estas fecha con todas estas circunstancias entendemos nosotros que debe ser retirado

todos los grupos de la cámara salvo el partido nacionalista vasco en todo caso señor uribe normalmente usted y yo discutimos mucho creo que tiene la oportunidad en este segundo turno de plantear
argumentos en relación a estas cuestiones que le he planteado gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria llanos andrea zurea da hitza

gracias de nuevo señora presidenta mire señor uribe etxebarria no es que me vaya a meter mucho

y si la iniciativa es ridícula o no eso cada cual lo valorará

ni que niegue que a veces es bueno llegar acuerdos y cambiar de idea en política

son las mismas que dije en la comisión antes de que se presentase esta iniciativa

usted ha hablado antes de entrar en las descalificaciones ha teorizado sobre lo que es un contrato programa

de un contrato programa y le repito lo que he dicho en la primera intervención

en el que cada una de las partes establezca cuales son los compromisos y los contenidos que tiene que cumplir puede ser bueno

plurianual para dar una estabilidad también pero si eso es así por qué no se hace

en el primer año de legislatura por qué y me imagino que me va a decir lo mismo

no había certidumbre económica y ahora la hay dígaselo al señor gatzagaetxebarria porque él no lo tiene tan claro y el señor lehendakari tampoco ahora hay

que de aquí a cuatro años los ingresos que se van a producir son realmente ciertos y usted me hablaba de que hay que ver el contenido de si yo sé cuál es contenido o no sé el contenido del contrato programa hombre habrá que ver

el compromiso del gobierno está claro poner dinero y sobre todo está claro el objetivo de este contrato programa que es que con las dificultades y el déficit continuo que todos los años tiene e i te be y no me diga que no hay déficit claro no hay déficit porque luego viene papá gobierno al final

pero con los problemas económicos que tiene por las pérdidas que está teniendo en publicidad

tener esa financiación pero habrá que ver cuáles son las obligaciones que tiene e i te be y a ese respecto

se pone sobre el papel la apuesta por el euskera y yo le he dicho en alguna ocasión si algo tiene sentido en e i te be como servicio público

porque ninguna cadena privada probablemente va a apostar por una televisión en euskera y es como servicio público etb tiene que darlo

que la televisión en castellano y le voy a poner un ejemplo que se puso en el propio consejo de administración en el que usted estaba en unas elecciones cuando se estaban comentando la noche electoral

se puso programación enlatada y eso no es tener la misma calidad en euskera que en castellano luego el compromiso después está muy bien

pero luego hay que cumplirlo y con relación a la veracidad la imparcialidad oiga de verdad y no me venga con que somos líderes en el teleberri porque ser líder no significa

y no me diga que salimos todos los grupos porque tampoco es garantía ya se lo dije algunos grupos de la oposición para lo que nos dedican el minutaje se lo ahorran se lo ahorran

de compromisos en un papel y quien presenta esos compromisos es una dirección

los ha cumplido ninguno de esos principios los ha cumplido

que pueda estar autorizada sí porque es la dirección actual de e i te be y la consejería actual que están legitimadas no no y además además de no tener legitimidad lo hemos expuesto todos aquí el modelo actual de e i te be está en absoluta crisis está desgastado y agotado

un contrato para cinco meses lo que falta para en teoría para terminar la legislatura o seguir con el que estamos

íntegra en la legislatura siguiente eso es comprometer si eso

no quiero ni pensar no hay cielo suficientemente alto para que el grito llegase nada más muchas gracias eskerrik asko llanos andrea

gero y ante la impaciencia del señor maneiro de saber el sentido de nuestro voto y la perplejidad que le ha causado el discurso al señor

para que el contrato programa cambie para que cambie de contenido no para que se deje en un lado o en otro lado porque lo que tenemos que tener claro es que

está teniendo un discurso bastante claro respecto a e i te be respecto al funcionamiento de e i te be y de cómo se están haciendo las cosas en e i te be y creo que

pero la crítica esa automáticamente no conlleva a juntarnos con vosotros

en cuanto a e i te be en cuanto a todo lo demás bastantes más pero en cuanto a e i te be

nosotros creemos que e i te be es necesario para este pueblo

que e i te be debe realizar una función pública debe realizar

aportar debe de contribuir a la normalización del euskera etcétera etcétera etcétera y creemos que tanto el partido popular upyd y a veces el partido socialista también están en una estrategia continua de acoso y derribo a e i te be

no vamos a participar en esa estrategia de acoso y derribo continuo contra e i te be no lo vamos hacer y la crítica nuestra en el anterior turno también

hacer es eso hay una crítica pero al igual

intentamos que esa crítica sea constructiva e intentamos decir

señora llanos la verdad es que me tienta mucho el

y vería usted como desde un punto de vista profesional y relativamente objetivo iba a avalar sin lugar a dudas este contrato programa entre otras cosas porque bastante tuvo que sufrir el hecho de poder o no poder contar con

cuando gobernaba el partido socialista con ustedes con su apoyo déficit es el de televisión española no el de etb ni el de e i te be no me

eso ya lo hace habitualmente y hombre líder líder en informativos es cuando menos garantía de credibilidad

es un tesoro impagable yo estoy un poquito preocupado porque no se si se entiende cuál es la verdadera naturaleza del contrato programa

la calidad ni la imparcialidad de las informaciones que se dan

es que no es eso pero no es eso ni en este contrato programa

entonces yo lo que pido es un esfuerzo por intentar entender cuál es la verdadera naturaleza del contrato programa y no exigirle más de lo que realmente es

es básicamente unas determinadas horas de programación que a cambio de una determinada financiación las distribuye por determinados objetivos con una determinadas misiones y con una serie de compromisos que en este caso son once

según idiomas según lenguas que efectivamente eso podríamos hablar porque no es un teman nuevo por tanto esa es la autentica naturaleza del contrato programa yo sí le he respondido señor maneiro quizá no le he citado simplemente igual por aquello de que el señor unzalu les ha embelesado y efectivamente porque ustedes proponiendo un contrato programa para cinco meses lo cual me parece profundamente ridículo es una propuesta decepcionante y ridícula

qué ha hecho la dirección de e i te be pues la dirección de e i te be como el gobierno vasco y el departamento de la consejera uriarte lo que han hecho es asumir su responsabilidad

y el mejor futuro posible a e i te be y en esa labor uno de los instrumentos fundamentales que fuimos pioneros aquí y que utilizan todas las radio televisiones o si quiere grupos multimedia de carácter público

y lo que este gobierno y esta dirección de e i te be ha conseguido es recuperar el carácter plurianual del contrato programa lo cual es yo creo que un auténtico triunfo y para todos aquellos

una consideración institucional más allá de otro tipo de críticas más allá de otro tipo de desacuerdos de e i te be deberíamos estar contentos

el contrato programa se puede cambiar si ustedes lo hicieron señor unzalu

con la pena que llevaba el señor surio por esas modificaciones y por no

de un contrato programa de carácter plurianual se puede modificar y se puede modificar al alza aurrekontuen eztabaida etortzerakoan

perfecta empatía señor unzalu no son argumentos realmente

de solidez lo que hay es una discusión sobre todo por una cuestión de disponibilidad financiera pero si ustedes lo sufrieron

si le quitaron insisto el carácter plurianual al contrato programa una de sus características fundamentales

es un esfuerzo por parte del gobierno vasco y de la dirección de e i te be para en esos compromisos exigencias responsabilidades mutuas

el contrato programa asumir cada cual sus responsabilidades y de la misma manera que usted se enfadó lo cual es

porque este año e i te be dispone de un presupuesto un poquito mayor

y resulta que se enfada o se molesta porque en los próximos años hay un determinado compromiso para que e i te be disponga de más financiación

consideramos a e i te be como uno de los pilares fundamentales del autogobierno vasco porque en un mundo abierto globalizado donde las informaciones

son cánones culturales el que un pueblo como el pueblo vasco

en la diferente oferta a la que tiene acceso de un grupo multimedia de carácter público que impulse en euskera que sea en euskera impulse la cultura vasca y dé la visión de las cosas de su realidad

es algo fundamental y es un derecho que tenemos como pueblo que desde el año mil novecientos setenta y tres

mil novecientos setenta y tres está aceptado a nivel mundial por tanto todo lo que sea trabajar en favor de e i te be de su presente y de su futuro va a contar con nuestro apoyo y ustedes dejen de poner palos en las ruedas

ya les queda poco solo algunos meses para seguir con esa oposición de tierra quemada que algún día tendrán que explicar por qué ese cambio cuáles son las verdaderas razones

es una sociedad que se crea en dos mil uno teóricamente isiltasuna mesedez y digo bien teóricamente para la promoción del aeropuerto de bilbao con un capital

y en su constitución participan la cámara de comercio el gobierno vasco

de dos mil cuatro el de erandio desde su constitución ha recibido

su director general jon gangoiti que ha ostentado distintos cargos públicos en su partido

la remuneración recibida por este trabajador entre los años dos mil uno y dos mil catorce ha sido

y eso que los problemas financieros de esta sociedad han sido constantes y sus gastos también desde el año dos mil nueve se empieza ya a generar de forma progresiva un déficit importante la razón es bien clara se reducen los ingresos

los ingresos habían sido recortados pero frente a ellos los gastos para mantener su estructura se incrementan

así dichos gastos ascienden en dos mil diez a doscientos cincuenta mil euros entre los que acaba de destacar ochenta y dos mil euros del sueldo del director

en varios entre los que figura una revista y una página web en dos mil once los gastos

por ello se decide finalmente disminuir el capital social transformarlo

y seguir inyectando más dinero público después de ese año y a pesar de como digo más aportaciones de dinero público de la condonación de una deuda por parte del gobierno vasco

aportaciones que han ido disminuyendo pero esta disminución no se ha acompasado con una contención del gasto

solemos decir todos que hay que ajustarse el cinturón pero señor gangoiti solo se debía ajustar el cinturón cuando viajaba en avión y por obligación porque desde luego en tierra y en lo relativo a los gastos de la sociedad el cinturón lo tenía absolutamente desbocado por ejemplo en su propio sueldo en el año dos mil doce a pesar de los problemas económicos se sube

y ese mismo año los gastos de viaje y de representación se incrementan en un cincuenta por ciento

cuando pregunté a la señora consejera datos de los gastos del año dos mil uno y dos mil catorce tenemos que se ha gastado sesenta mil euros en publicidad y trescientos sesenta y cinco mil euros en viaje

veintidós mil quinientos euros en artículos de regalo veinte mil euros en móvil diecisiete mil quinientos euros en restaurantes dieciséis mil cuatrocientos euros en club privados siete

en taxi siempre con el mismo dos mil euros en una bodega

billeteras de piel bolígrafos a treinta euros la unidad mp cuatros a setenta y cinco euros la unidad paraguas a veinticinco euros eso es

y los viajes y comidas del señor gangoiti tampoco eran austeros a getaria viajaba

que le lleva espera mientras come y le vuelve a traer se gasta casi cuatrocientos cincuenta euros más que en un billete de avión a madrid

de la media y las cuentas en restaurantes tampoco son livianas el menú del día no le iba era más bien dado al chuletón al bogavante al besugo como dijo mi compañero al señor gangoiti la ruta del bacalao no le gustaba lo que le gustaba era la ruta del bogavante ha tenido saldos negativos en la tarjeta de la sociedad que él manejaba

de los gastos que cargaba a la misma y ante esto hay que preguntar de verdad guardan relación todos estos gastos con la actividad de la compañía de verdad son necesarios de verdad son razonables en la contestación a la pregunta que yo formulé en el pleno de control

que la actividad de la sociedad está relacionada con favorecer el establecimiento de nuevas compañías de celebrar convenciones con órganos de decisión de compañías aéreas internacionales que luego han abierto

y en el acto de vuelta de esta compañía desde luego el señor gangoiti no estaba o también que el logro de compañías como lufthansa eligiesen el aeropuerto de

porque convenciones con lufthansa ha habido varias convenciones que han costado mucho dinero a los vascos

en primer lugar para conseguir en su caso que lufthansa estuviese en bilbao es necesario gastar

para doscientos personas es necesario llevar a los alemanes a una bodega del marqués de riscal y gastarse casi tres mil euros es necesario llevarles a comer al guria

además de que no es necesario en segundo lugar hay que decir que lufthansa lleva establecido en loiu más de veinticinco años lleva en bizkaia desde el año mil novecientos noventa

antes que bilbao air y antes que el señor gangoiti también señaló la consejera que la sociedad se encargaba de ampliar el área de influencia del aeropuerto

si dentro de esa área de influencia se puede incluir también

desde allí a coger un avión aquí porque

o de una comida bien regada con champan francés en un restaurante en lugo entra

bastante razonables que señaló la consejera si desde luego entra dentro de ese concepto de bastante razonable es que la señora consejera y este grupo tenemos conceptos distintos de lo razonable pero una prueba de que no se consideraba tan razonable

en la misma se señala que hay que aplicar racionalidad y austeridad en los gastos

de dichos gastos y de los resultados reales de esta sociedad prueba palmaria de que hasta ahora

también contiene otra cuestión y es que no ha habido forma de valorar la eficacia de esta sociedad y por ello se solicita que se realice

y también que se establezcan sistemas para evaluar los logros que se consigan así como la eficacia y la eficiencia de la intermediación

quince años más tarde después de quince años funcionando ahora se plantean hacer un plan de negocio y un sistema que permita medir la eficacia de la sociedad qué quiere que les diga a esto se le puede aplicar un refrán bien castizo que es a buenas horas mangas verdes

lo de nunca es tarde si la dicha es buena pero es que la dicha no es buena la dicha no es buena porque la eficacia de esta sociedad es nula

en duda por el propio tribunal vasco de cuentas textualmente el tribunal señalaba que no existen indicadores que permitan relacionar las actividades detalladas y la evolución comercial del aeropuerto de bilbao además de poner de manifiesto

de los gastos y de la falta de eficacia de la sociedad en los años dos mil once y dos mil doce el gobierno vasco entonces con los socialistas al frente canceló la subvención que otorgaba la sociedad y esto trajo consigo problemas financieros para la misma

y para tapar ese agujero se tuvo que rescatar aquí sí rescatar a la sociedad la llegada al gobierno del partido nacionalista vasco

y el rescate como digo de la sociedad aportando más fondos se volvió

dudamos si a lo que se volvió es a la justificación de su actividad que no ha sido clara desde el origen de la misma ya expresé los motivos que llevaron a crear esta sociedad

no sabemos si era para poner la txapela a la promoción del aeropuerto que no a la gestión porque la gestión no es competencia de nuestra comunidad autónoma lo cual no sería raro porque poner txapelas a organismos es algo que les gusta mucho al partido nacionalista vasco no hay más que ver

dos veces porque nos digan si mañana va a llover o va a hacer sol pero creemos

pesaba otra razón más y era buscar una ubicación laboral a un excargo público nacionalista y este objetivo desde luego se cumplió con creces y ahora en lo que estamos expectantes desde el grupo popular es quien va a heredar el cargo del señor gangoiti cuando este se jubile

hereditarios igual que la monarquía a la falta de control en los gastos excesivos y a la falta de utilidad de la sociedad hay que unir la opacidad la falta

pone de manifiesto que se realizan contrataciones a dedo y que en el año dos mil doce carecía de perfil de contratante tal y como se exige en la ley de contratos del sector público

se le ha suministrado información el grupo popular a través de nuestro portavoz en las juntas generales de bizkaia solicitó poder acceder a la información

y se le dijo que tenía que ir a verla directamente a la sede de la sociedad

acompañándole para poder tener conocimiento de la documentación porque ya había presentado

en esta cámara porque este tema se estaba tratando aquí y en nuestra función de controlar el gobierno que aporta fondos a esa sociedad queríamos también conocer cuáles eran esos gastos a pesar de que el representante de la cámara de comercio el señor landeta sabe perfectamente que soy parlamentaria de esta cámara

en el asunto estaba justificado como digo por la labor de control sobre fondos que aporta el gobierno vasco literalmente de las oficinas de la cámara y me impidió tener acceso a la información y el acceso a la información fue como si se estuvieran mirando los fondos reservados creo que mirar fondos reservados

que comprobar los gastos de esta sociedad todo el tiempo que se miró la información había un vigilante detrás mirando que es lo que se miraba valga la redundancia por tanto estamos ante una sociedad

y ante una sociedad cuya actividad está absolutamente cuestionada hay grupos en esta cámara que compartían

embaucados los socialistas no tenían tan claro como parecen tener ahora la relación de los gastos de la sociedad con la actividad de las mismas así tras el informe del tribunal vasco de cuentas pidió

la comparecencia del diputado foral de promoción económica para que diese explicaciones de dicha sociedad también hubo una proposición

pidiendo la disolución de la sociedad y entonces el señor torres intervino para poner en duda la utilidad de la misma

y para la disolución de la misma hoy en cambio aquí plantean junto con el grupo nacionalista continuar con la misma y hacer ahora sí

quince como digo quince años más tarde desde nuestro grupo consideramos que no es necesario una sociedad específica para la promoción del aeropuerto de loiu y pedimos que el gobierno vasco plantee su disolución

retire su participación accionarial asimismo solicitamos la reprobación de la gestión económica llevada a cabo por su dirección que no se ajusta siendo

cualquiera hay que valorar primero si es necesario que exista y después

sociedades para la creación de aeropuertos con mayor o menor presencia pública

y de forma muy acusada en españa quizás porque tenemos más aeropuertos que la media y también algunos ejemplos que sinceramente son para olvidar tan solo en euskadi

para la promoción de foronda integrada por la diputación la cámara de comercio y el gobierno vasco en gipuzkoa centrada en el aeropuerto de hondarribi y en la que están además los ayuntamientos de irun y san sebastián

creada en el dos mil uno por la diputación el gobierno vasco la cámara de comercio y los ayuntamientos de loiu derio sondica y zamudio bilbao air cuando se creó

y promover que nuevas compañías establezcan su centro de operación en loiu por lo tanto sobre el papel su utilidad parece fuera de duda

la disolución de la sociedad porque considera que no cumple los fines para los que fue creada

con eh bildu que igual esa es noticia hablando en serio si se estima que una entidad

parece de la que no se discute su utilidad no cumple con la finalidad establecida lo razonable en primer lugar es tomar medidas para corregir la situación y conseguir que la cumpla

no voy a negar que durante muchos años usted lo ha recordado mi grupo ha tenido muchas dudas sobre la eficacia y el rigor en la gestión que desarrollaba en bilbao air su director y así lo manifestamos reiteradamente en las juntas generales de bizkaia sin que el pnv

se diera por aludido en ningún momento por eso nuestro grupo solicitó hace ya tres años

que el tribunal vasco de cuentas fiscalizará las cuentas de bilbao air hasta entonces sometidas a auditorías externas contratadas por la propia sociedad y una vez realizada la auditoría hicimos que la diputación explicara su resultado

en su informe el tribunal vasco de cuentas concluyó que la sociedad cumplía razonablemente la normativa legal que regula su actividad económico financiera y no puso objeciones

y a las operaciones financieras realizadas en ese ejercicio sin embargo como entendíamos que no siempre el concepto de legalidad coincide con el de transparencia y eficiencia que son también fundamentales planteábamos dudas y por eso al final ha tenido que llegar un diputado foral socialista el señor vicente reyes al que conocen de sobra en esta cámara titular ahora de transportes

en el funcionamiento de bilbao air es lo que hizo el señor reyes en la última reunión del consejo de administración de esa sociedad de cuyos resultados por cierto informó seguidamente

pero que haya concordancia entre los objetivos propios de la sociedad y los gastos realizados la mayoría de ellos en publicidad asesorías contactos con operadores líneas aéreas ferias etcétera etcétera

y por eso con una visión positiva creemos que es el momento

para que cumpla mejor sus objetivos y para que su gestión sea transparente y además evaluable una demanda que no es exigible por cierto solo

también porque aquí estamos en el parlamento vasco a las que operan en foronda

por eso en la enmienda que hemos acordado con el grupo nacionalista solicitamos que los representantes del gobierno

de las tres sociedades planteen la elaboración en todas ellas de un plan estratégico que incluya un plan de negocio

y sistemas de evaluación que permitan definir los logros que se establezcan además mecanismos para evaluar la eficacia la eficiencia y la utilidad de su actividad aplicando criterios de racionalidad y austeridad en el gasto y de transparencia en la explicación pública de los mismos y que se articulen y esto nos parece muy importante fórmulas de coordinación de colaboración y actuaciones conjuntas con otros organismos como aena que no participa

en esas mismas sociedades porque cada una de ellas tendrá que velar por los intereses del aeropuerto del que se ocupa sí pero sin perder de vista el conjunto de los intereses generales salvo que queramos

los tres reinos de taifas de cada uno de los territorios que componen la comunidad autónoma los tres territorios los tres aeropuertos están en el mismo país

y ni pueden ni deben competir haciéndose la guerra mutuamente sino aprovechando los nichos en los que son más fuertes creemos que ese es el camino en los tres casos

si no se da la coordinación entre las tres sociedades si no se consigue

como lógicamente uno de los elementos principales creo que debiéramos plantearnos seriamente si esto no funciona la existencia de las tres sociedades de promoción aeroportuaria
que existen en euskadi ese es el criterio de los socialistas vascos eskerrik asko pastor jauna

de donde no hay no se puede sacar y calumnia que algo queda con estas dos frases hechas o con estos dos refranes que veo que a usted también le gustan resumiría yo

más claro imposible acusar es muy fácil y hacer un daño gratuito innecesario también pero por mucho que se empeñen de donde no hay no se puede sacar en qué se basan para realizar las afirmaciones que justifican según ustedes esta proposición no de ley para esta pregunta la respuesta es clara y concreta

y en el actual gobierno vasco lo que ustedes tienen en su casa corrupción

y mal uso del dinero y de los recursos públicos por desgracia su formación política está hasta arriba de casos de corrupción e intentan salpicar a los demás

sin pruebas eso es tergiversar manipular ensuciar faltar a la verdad sin pruebas sin argumentos sólidos y sin justificaciones probadas

por mucho que se intente por mucho que se inventen acusaciones por mucho que usen falsos argumentos por mucho que les guste tener razón la verdad es tozuda y acaba saliendo y la mentira tiene las patitas muy cortas

en la gestión de eaj pnv y en el actual gobierno creo que les conduce a creerse sus propios argumentos argumentos que caen por cierto por su propio peso

por qué lo plantean solo con bilbao air el objetivo es calumniar porque como he dicho calumnia que algo queda

a ver si conseguimos tapar o camuflar lo que tenemos en nuestras propias casas nuestras propias vergüenzas tapar lo nuestro a base de salpicar a los demás

y aunque se demuestre que nada era verdad y que nohabía nada de lo que se denunciaba después

queda ahí y desde luego también la alargada sombra de la sospecha

bilbao air promociona el aeropuerto entre los prescriptores

se mantiene una estrecha colaboración con aena tanto a nivel de aeropuerto de bilbao como en madrid con

para detectar nuevos posibles destinos y nuevas compañías y hacer todo lo necesario para mantener el buen funcionamiento de las que ya operan en este aeropuerto el mantenimiento y actualización de la web además de promocionar bilbao air difunde la información completa sobre las actividades servicios y ofertas disponibles desde el aeropuerto

cuenta con un apartado para conocer qué es bilbao air sus funciones y objetivos y un apartado de noticias se facilita información sobre el aeropuerto con estadísticas promoción a bilbao y tiene links hacia aeropuertos líneas aéreas y agencias de viajes

estudia tendencias y cambios en el tráfico de pasajeros se establecen perspectivas para los próximos años retos objetivos y acciones necesarias

en su crecimiento igual que el internacional también se han incrementado los destinos internos de negocios los destinos internos vacacionales y también los internacionales durante el año dos mil quince se han establecido nuevos destinos regulares como bilbao londres gatwick con vueling bilbao bristol con easyjet

bilbao praga y bilbao roma bilbao bruselas bilbao santiago y bilbao palma

sortu beharko quién ha estado hasta hace poco en via gasteiz

nosotros junto con el grupo socialista pedimos al gobierno vasco que continúe desarrollando los objetivos además de bilbao air en via y en ortzibia

la disposición de la cámara de comercio a ayudarme en esta revisión ha sido plena y también los gastos que he visto se aplican a actividades propias de una sociedad de promoción del aeropuerto

se dirigen a actividades relacionadas con la relación con operadores aéreos participación en ferias promoción del aeropuerto publicidad corporativa etcétera

todos los años se hacen auditorias independientes y por citar expresamente la del dos mil catorce la última

del patrimonio y de la situación financiera de la sociedad
y también el tribunal vasco de cuentas públicas isiltasuna mesedez que ha

dice exactamente lo mismo por cierto el tribunal se pronunció por unanimidad y estaba presidido por don jose ignacio martínez churiaque propuesto por el partido popular

hobekuntzarekin ados gaude favorecer el desarrollo de nuevas líneas y frecuencias que permitan mejorar la conectividad externa de bilbao

mejorar la conectividad del aeropuerto con el entorno ampliando el área de influencia favorecer el establecimiento de centros de operaciones de nuevas compañías en bilbao

fomentar la calidad de vida de los habitantes de los municipios en los que tiene influencia

cualquier actividad de promoción de las ventajas del aeropuerto así como de difusión de una imagen positiva de su entorno

interinstitucional y público privada para el cumplimiento de los fines de la sociedad para poder cumplir con todos estos objetivos son necesarias la comunicación

no es un paraíso fiscal sino que tiene una cultura tributaria distinta

bilbao air no es un chiringuito pnv y pse tienen una cultura de la responsabilidad

hoy no hablamos aquí de planes estratégicos ni de racionalidad ni de nada que no sea revisar lo que ha estado sucediendo en bilbao air durante catorce quince años tiene tela que el que presenta la iniciativa sea el grupo político que ha convertido la corrupción la evasión fiscal el chanchulleo el amiguismo el clientelismo y la política del pelotazo

desde expresidentes de gobierno como aznar a alcaldes desde ministros en funciones hasta concejales como maroto con los alquileres de la calle san antonio de gasteiz

y la incorrecta utilización de una empresa de capital público como bilbao air en estos tiempos convulsos en lo político estas cosas suceden egia esan gaur

durante estos años ha sido muy interesante emplear mi tiempo en ver quiénes son las personas que se encuentran en los consejos de administración de las empresas con las que contrataba

vidorra que ha tenido el señor gangoiti gracias al dinero público uste dut zuek eta kanpoko jendeak hobeto ulertuko duela gertatu dena datuak aipatzen badira ante los datos no se puede refutar o son ciertos o no lo son y los que yo les vengo a dar aquí son extraídos de documentos oficiales de bizkaia y de bilbao air el dinero público que ha entrado son unos dos coma cinco millónes de euros desde dos mil uno en que se crea

así que a partir de ahora me referiré a gangoiti como aquel que vive del mecenazgo del pnv con dinero público pues bien este señor ha venido a recibir en salarios aproximadamente un millón de euros lo cual quiere decir que de cada diez euros de dinero público que llegaba a bilbao air cuatro eran

en el inicio de la sociedad haya por el dos mil dos se contrataron a varias empresas de recursos humanos por valor de decenas de miles de euros recordemos que solo ha habido un contratado durante todo este tiempo por lo que la gestión de los recursos humanos

de automotivación gorroneo y pago a empresas amigas beste gastu harrigarri bat publizitate gastuak izan dira

allí se agrupan conceptos tan variados como empresas de publicidad empresas de regalos empresas de ropa

privados caros compras en bodega taxis aerotaxis

pues bien hay varios datos que son muy curiosos por un lado

que tienden también a tener muy buenas relaciones con el actual gobierno vasco con la diputación de bizkaia y diferentes ayuntamientos del pnv tienen

y algunos de ellos son reconocidos militantes del pnv curioso también es curioso que dichas empresas de publicidad en algunos casos carezcan de página web

no sé cómo empresas de publicidad pueden conseguir tantos contratos con la administración pública y empresas adyacentes si no fuese por sus contactos políticos

estén plagadas en sus consejos de administración por los responsables de los propios medios de comunicación pudiera parecer que fuesen empresas pantallas

la verdad es que es un tema curioso el de las empresas de publicidad es también curioso que sin un plan estratégico hasta el día de hoy el subvencionado gangoiti para el cual se creó este chiringuito ad hoc gastase hasta el año dos mil catorce más de trescientos setenta mil euros en viajes

de ampliar su experiencia vital y visitar lugares interesantes no creo que un viaje a avilés

pues bien este señor al que el pse y pnv amparan y mecenan

sin un plan estratégico ni nada pero con la cartera llena y la ilusión de quien sabe que está todo pagado en su tranquilidad gastó

y si hacía falta se llevaba según las explicaciones que ha dado bilbao air a toda la plantilla o delegación de lufthansa de comida por ejemplo datos objetivos llama la atención también la relación existente con una empresa de madrid que vende corbatas y pañuelos

no solo en euskal herria sino también en el reino vecino de ahí sus gastos onerosos en hoteles y restaurantes carísimos allí donde fuese

o en aerotaxi por tres mil quinientos euros ejemplo de mesura austeridad y racionalidad

que todavía cobran la ayuda de garantia de ingresos en gipuzkoa y a las que el pnv quiere dejar sin la prestación y es que lo importante es lo importante

tras la ayuda de este gobierno y del resto de los socios inyectando más dinero público en dos mil catorce

desde dos mil doce hasta dos mil catorce se redujo drásticamente sin embargo el sueldo ni bajo ni se dejó de pagar

en dos mil catorce el propio pse pidió la disolución de la sociedad pero por lo que parece unos parques de petanca

este tema también se ve con otros ojos bukatzen goazela

pero les puedo demostrar todo esto con datos la persona de la que les hablo se define en su perfil de likedin como y leo textualmente

así como emailing y presencia y difusión en redes sociales de empresas e instituciones

la han visto de verdad hay miles de blog gratuitos con mejor pinta

ustedes han mirado la actividad de bilbao air en las redes sociales se lo digo en facebook tiene a día de hoy trescientos nueve personas a las que les gusta la página oficial

a qué se ha dedicado qué contactos tiene esta persona

todos son cómplices para finalizar otro dato curioso pero hay muchísimos que alguien aquí me explique cómo puede ser que el abc

en publicidad qué clase de promoción es esa

me imagino que el grupo noticias también recibían directo por publicidad directamente sin pasar el filtro de las empresas de publicidad de las que antes he hablado

por lo menos me parece muy curioso ondorio moduan bukatzeko gure zuzenketa mantendu egiten dugula iragartzen dizuet

berez nahiko lotsagarria iruditzen zaigu la enmienda presentada por pnv y pse demuestra que en este país al igual que en el de nuestros vecinos de abajo lo importante no es si se roba o no sino quien lo hace y dependiendo de eso las consecuencias son diferentes

lo ha sido gracias a la personalidad jurídica que se le dio a esa empresa creándola como sa y posteriormente scincuenta para que la fiscalización publica y el control fuese más difícil

por ese dinero público invertido en la sociedad lo ha sido gracias a que existe un pacto entre el pnv y el pse que impide que se fiscalizado fiscalizar no si el gasto ha sido realizado sino si ese gasto ha sido apropiado políticamente o no lo ha sido y yo les digo que bilbao air es el ejemplo perfecto de clientelismo

y fraude en la gestión es una vergüenza que desde una institución pública se permita y sean ustedes cómplices de esta aberración y de esta

muchas gracias presidenta ya se ha dicho bilbao air es una sociedad creada en dos mil uno para la supuesta promoción del aeropuerto de bilbao

y los ayuntamientos de la zona desde entonces es una sociedad que ha consumido

de dinero público ha sido financiada únicamente por el gobierno vasco y por la diputación foral de bizkaia dado que los ayuntamientos no realizan aportaciones

y gastos generales y carece de ingresos propios el gobierno lópez cancela la subvención dado que la sociedad no justifica ni los gastos ni la actividad

de la comunidad autónoma cubriendo además su déficit anterior bilbao air es una sociedad con un único empleado jon gangoiti

según se desprende de las informaciones publicadas en los últimos tiempos conocidas gracias al buen trabajo político del señor ruiz en la juntas generales de bizkaia

ha generado unos abultados gastos en viajes regalos y hoteles durante todo este tiempo el único empleado efectivamente subvencionado de la sociedad que disfruta de un sueldo de ochenta mil euros ha sumado gastos por valor de quinientos noventa y dos mil euros en publicidad y propaganda

hoteles veintidós mil quinientos en artículos de regalo dieciséis mil cuatrocientos en clubs privados siete mil doscientos en taxi

euros en artículos de ropa entre otros esto al partido nacionalista vasco le parece

le parezca normal es lógico es su forma habitual de proceder en dos mil catorce en tribunal vasco de cuentas públicas destacó su nula coordinación señaló que desconoce la utilidad de la sociedad y recordó que gobierno vasco y diputación foral de bizkaia tuvieron que tapar en dos mil doce un agujero de cuatrocientos mil euros y condonarle una deuda ochenta y cuatro mil euros ochenta y ocho mil quinientos los intereses es decir hablamos de sociedad pública creada

con un solo trabajador del partido nacionalista vasco que únicamente recibe fondos de instituciones controladas por el partido nacionalista vasco que ha incurrido en un inmenso derroche

es nula o no puede delimitarse debido a su nula coordinación

teniendo todos estos datos y todos los datos

es evidente que no queda otra opción que apoyar la iniciativa del grupo popular y pedir la disolución de la sociedad yo cuando vi esta iniciativa

y qué hará el partido socialista y la respuesta ha sido la misma

de parlamento la misma efectivamente el partido socialista de euskadi otra vez se va a aliar con el partido nacionalista vasco para tapar

y su desvergüenza y no han llegado a una transaccional conjunta no han firmado uno la del otro

han firmado incluso una transaccional conjunta para que efectivamente esta sociedad siga adelante y haya un amigo del partido nacionalista vasco que siga viviendo

de todos los ciudadanos vascos y efectivamente presentan esta enmienda conjunta ahora proponen lo que se supone que debe hacer esta sociedad y las otras dos sociedades que tiene un objetivo parecido ahora plantean esto

ahora plantean el establecimiento de mecanismos que permitan testar la eficacia y eficiencia de la intermediación de estas sociedades ahora plantean

después de habernos robado durante todos estos años ahora plantean el establecimiento de mecanismos que permitan una dación de cuentas de los gastos y de los propios resultados reales de estas sociedades ahora proponen promover

interinstitucional y público privada para el cumplimiento de los fines de estas sociedades y qué han estado haciendo hasta ahora durante todos estos años esto no se cumplía

de esta sociedad pues sí efectivamente firman una transaccional conjunta el señor

suele decir en estos debates donde en último momento no sé si está ya todo pactado deciden proteger al partido nacionalista vasco si no se coordinan con aena efectivamente estaremos atentos y

qué ocurre entonces con lo que ha pasado durante todos estos años quién es el responsable político de todo este derroche de dinero público en fin

datos objetivos en relación a lo que ha hecho esta sociedad durante todos estos años son datos objetivos el dinero en qué

el derroche de dinero público la mala gestión datos perfectamente objetivos yo no quiero calumniar quiero hacer preguntas señores del partido nacionalista vasco del partido socialista de euskadi cuántas sociedades de este tipo

en euskadi cuántos colocados del partido nacionalista vasco y del partido socialista de euskadi viven de la sopa boba cuántos subvencionados mantienen a cargo y a costa del dinero de los ciudadanos vascos

señores del partido nacionalista vasco cuánto dinero público nos han robado a los ciudadanos vascos nos siguen robando y nos van a robar en el futuro

gracias de nuevo señora presidenta señora juez ahora

un refrán voy a utilizar una expresión que suelen usar mis hijos que es que me ha dejado usted muerta muerta

es complicado y cuando

una defensa es complicada pues es tinta del calamar verdad insulto al de enfrente descalificación y así salgo del atolladero usted dice ha dicho de donde no se puede sacar qué no hay despilfarro de verdad lo que le he dicho antes no solamente tenemos un concepto diferente de lo razonable es que también tenemos un concepto diferente del despilfarro que no hay despilfarro de verdad usted me está diciendo que el señor gangoiti a costa de todos se va a comer a isla se come chuletón no en isla fue el bogavante se con champán francés eso sí nadie sabe para qué va a isla será para que los de isla vayan al aeropuerto de loiu y eso no es despilfarro de verdad en vez de utilizar un merchandising normal el que en los grupos estamos acostumbrados que hacemos en elecciones esos bolis de plastiquito

y eso no es que donde hay no se puede sacar eso está en la contabilidad conseguido con mucho trabajo eso sí

es un lema pero que luego aplicarlo es otra cosa pero eso

y de verdad el sibarita culinario que es el señor gangoiti ya le digo una pechuga a la plancha no aparece no

no aparece una pechuga a la plancha todo es chuletón bogavante

así eso no es despilfarro cuando se trae a lufthansa a papo de rey

y mire usted ha salido aquí y por eso también me ha dejado muerta porque ha llegado al acuerdo a la enmienda mire si ustedes están diciendo no sí todo funcionaba de maravilla

tenía un total sentido la sociedad pues si tiene sentido para que presentan ustedes la enmienda de ahora vamos a hacer un plan

de negocio ahora vamos a controlar los gastos ahora vamos a austeridad porque no creen en ello porque ustedes creen que lo han hecho fenomenal y que ustedes son del pnv y pueden hacer eso

pueden hacer eso y más lo hacen para salvar el papelón de que hoy aquí no se apruebe la iniciativa del partido popular

por cierto ustedes saben lo que pasa que hay un refrán que es

y eso son ustedes el partido nacionalista vasco puede hacer los gastos que quiera porque yo lo valgo

hombre y que es eso de que me pretendan controlar hasta ahí podíamos llegar a alguien del partido nacionalista vasco que no tenemos corrupción el señor de miguel debía de pasar por allí

por el tribunal superior de justicia pero tampoco no yo puedo hacer lo que

puedo colocar a quien quiera y lo de dar explicaciones

si me da la gana y con un vigilante detrás y hay que hacer una labor detectivesca pero sabe lo que pasa que lo peor siendo malo el despilfarro siendo malo

la falta de utilidad de eficiencia y eficacia lo peor es como le digo que ustedes creen que pueden hacerlo porque tienen derecho a hacerlo y lo peor es que ustedes socialistas

han pasado de pedir la disolución de la sociedad a presentar esta pantomima del plan de negocio igual que pasaron ustedes

por el tema de pinosolo a no ponerse de perfil a ponerse de espaldas pero es que es más usted señor pastor cuando se publica este tema

usted publica un tweet lo tengo aquí un

una pregunta o dos perdón por la expresión pero es que viene así

es bilbao air para qué sirve quién la paga aquí no lo tenían ustedes tan claro ahora ya tienen claro qué es bilbao air cuál es la diferencia el señor reyes
sentado en el consejo de la diputación foral de bizkaia eskerrik asko llanos anderea

zurea da hitza brevemente desde el escaño sin entrar en la descalificación del tú más
para el que algunos sinceramente no está demasiado legitimados en cualquiera caso nosotros mantenemos nuestro criterio es cierto

es cierto que pensamos que eso funciona si funciona

en la de álava de la que ustedes no habla nada por cierto que ustedes la llevaron durante mucho tiempo para poner vuelos en los que no montaba nadie

y en la de bilbao y hemos dicho en tribuna y lo vuelvo a repetir

las tres coordinadas y con aena con eficacia y transparencia y si eso no es así esta moción quedará sin sentido y nosotros pediremos que las tres que se habrá demostrado que no sirven para nada en ese supuesto se disuelvan y mantengo lo mismo que decía en ese tweet y mantengo lo que hemos dicho

respecto a esa enmienda y esa transacción yo entiendo que a usted le moleste pero lo mismo que le decía al señor oyarzabal

intervención de arriba abajo y no encontrará ni un solo insulto he afirmado cosas que por supuesto son verdad

pero la interpretación y la lectura que se hace de estos datos creo que no lo son tanto eso de ver la paja

no es nada bueno para la salud y desde luego nada recomendable

y lo que es peor confunde a la ciudadanía queriendo con esa mala intención

sufrimos demasiadas veces queriendo se han hecho y se están haciendo verdaderos esfuerzos por descalificar a este gobierno pero los vascos siguen confiando en él

les vuelvo a decir que donde no hay no se puede sacar y aquí desde luego no han demostrado nada por mucho empeño que se ponga no se ha demostrado nada las denuncias y acusaciones hay que demostrarlas pero nada

en quince años de actividad de la sociedad se han celebrado

por poner solo algunos ejemplos si esto no es actividad y promoción yo pregunto qué es es trabajo

en su día se le propuso que participase con el mismo porcentaje que la cámara de comercio que la diputación foral de bizkaia que el gobierno vasco y los ayuntamientos integrantes

también lo tendrían que hacer con otros cincuenta aeropuertos y que no era posible bilbao air pertenece al comité de coordinación aeroportuaria del país vasco

fuera de nuestra comunidad existe es real al contrario de lo que algunos y algunas les gustaría a juzgar por lo que hoy se ha dicho aquí

se colabora con aena si la auditoría no ha descubierto nada irregular

y estaba presidido por una persona elegida por los populares por qué no se centran en ordenar sus casas y dejar trabajar a los demás y no intentar enredar en lo que funciona en lo que aporta nuestra sociedad

aunque hay que reconocerles que esfuerzo ganas y empeño le ponen si no se descentrase tanto buscando lo que no hay seguro

los gastos que aquí se han comentado son gastos realizados durante casi dieciséis años de actividad

cuentas claras gastos justificados actividad y promoción demostrada lo contrario lo que afirma la proposición no de ley no demuestra nada conjetura falsedades y ganas de liar de enredar y de asustar que hay que mejorar de acuerdo en ello estamos

es que no lo décimos nosotros lo afirman las auditorías y el tribunal vasco de cuentas los datos que aquí se han dado los han visto las auditorías y el tribunal vasco de cuentas a lo mejor nosotros sabemos interpretar más o mejor estos datos agian

bai eskerrik asko como los datos son verdaderos el problema ahora

que son gastos de quince años claro y por eso yo le he dado las medias también

al año por ejemplo en viajes un año curioso dos mil trece apenas tiene actividad la empresa apenas en publicidad el gasto es

en viajes no el nivel de vida de esta persona se mantenía

de la empresa su nivel de gasto en sus cosas es decir en sus cenas comilonas y demás se mantenía es un subvencionado es un subvencionado público pero eso es un dato objetivo

año a año se han llevado un dinero eso también es un dato objetivo durante dieciséis años cierto

todos esos años me viene a la memoria una de esas empresas cuyo uno de los responsables en el consejo de administración es una persona del pnv muy conocida en bilbao

entre dieciséis años también pero es que una empresa en la que él también

otros datos más empresas no solo de publicidad

sin actividad ninguna porque no había un plan estratégico ni había objetivos medibles de qué me está hablando usted de datos no hay ni un solo objetivo medible ni uno solo me dice que ha habido cinco convenciones

en quince años eso es a una

todo un logro mientras tanto este señor seguía comiendo todos los días pero bien lo decíamos antes entre chuletones bogavantes y que no le faltase de nada

el problema es que esto a lo que huele es a una jubilación de oro

es una sociedad que no ha realizado trabajo alguno y solo hay que ver la página web es una vergüenza es una absoluta vergüenza cómo es esa página web para hacer de promoción de algo es una vergüenza

usted no ha podido entrar en esa página web porque si no no lo hubiese dicho aquí ha entrado y no le parece una vergüenza sinceramente qué le parece en serio qué le parece no no es que ya va en serio qué le parece usted cree que merece más de setenta mil euros

esa página web sinceramente despilfarro no me dirá que no ha habido más allá de la vidorra que le hemos subvencionado entre todos y todas

es un gran gestor esta persona aquí no estamos hablando como ustedes en su enmienda porque además ustedes en su enmienda lo bueno es que tanto el punto dos tres y cuatro reconocen que la gestión ha sido pésima

y ahora vamos a establecer los mecanismos que permitan evitar todo aquello que les estamos denunciando lo asumen y lo saben el problema es que es uno de los suyos y más allá

lo que podemos decir es que el problema lo tiene el pnv dentro porque seguramente de estas tendrán ustedes bastantes como ya se les ha pillado en alguna otra ese es su problema pero no tiene porqué defender aquí es decir el problema que estamos viviendo también en la política es que se defiende a los propios de una manera irracional y lo que debería haber traído usted aquí es asumir por un lado

malísima pésima que tienen que darle una vuelta y que seguramente tendrán que poner a otra persona y hacer un análisis que es lo que le pedíamos nosotros y nosotras en nuestra enmienda

qué es lo que pasa lo único que auditan es si el gasto queda reflejado y si esos gastos están bien contemplados o no

porque no tienen absolutamente nada con qué medirlo también lo decía el tribunal vasco de cuentas no se puede saber si sirven para algo o no porque tampoco

es que la actividad de esta empresa ha sido ninguna y el mayor problema que

se queda con la sensación después de estos debates es que aquí se puede hacer lo que quiera porque aquí todo el mundo se va de rositas no pasa absolutamente nada esta persona se ha llevado más de uno millón de euros en sueldo eso sí en quince años claro

le hemos dado una vidorra bastante buena y yo creo que una jubilación

de lo más digna esa jubilación que nosotros y nosotras queríamos para el resto de la sociedad y que ustedes se la han negado por qué porque no era uno de los suyos

sí señora juez me ha llegado al alma una afirmación que usted ha realizado no sé si dirigida

o a parte de ellos usted ha dicho que nos dediquemos a ordenar nuestras casas

usted ha dicho esto nuestra casa es euskadi el dinero público es de todos cómo que es esto que nos dediquemos a mirar nuestra casa tenemos que analizar qué es lo que hace el gobierno qué es lo que hace cada departamento qué es lo que hace cada sociedad pública qué es lo que hacen

institucionales del partido nacionalista vasco o de cualquier otro partido político allí donde dirigen y controlan el dinero público esa es nuestra labor fundamental como parlamentarios vascos por lo tanto nuestra casa es euskadi y nos dedicamos efectivamente a ordenarla y a tratar con estas iniciativas como esta y como otras a que haya la máxima transparencia de que no haya ni un solo

y de que nadie se lleve el dinero público que es de todos esto es lo que hemos hecho y a esto nos dedicamos esta es nuestra casa y por lo tanto vamos a seguir haciendo esa tarea

están claras claro la contabilidad refleja efectivamente los ingresos que ha tenido esta sociedad las subvenciones percibidas y los gastos

qué está usted planteando que efectivamente no se han manipulado las cuentas efectivamente como las cuentas están claras y las hemos comprobado

de que es un auténtico escándalo que se hayan dedicado tres millónes de euros a garantizar la vida de un amigo suyo es decir del partido nacionalista vasco por lo tanto no hacemos ninguna interpretación de los datos ninguna son datos objetivos lo que hacemos es sumarlos y décimos que esto es demasiado dinero público destinado a una sola persona y a una única

que no sirve para nada tal como expresó en su momento el tribunal vasco de cuentas públicas que desconocía cuál era su actividad cuáles son los resultados de esta sociedad puede explicarnos cuáles han sido los resultados qué es lo que ha logrado esta sociedad

permitir que haya un miembro del partido nacionalista vasco que efectivamente haya podido vivir durante largos años no hay resultados y por lo tanto todo esto es lo que estamos denunciando decía el señor lópez de munain que

no es que el problema lo tenemos todos los demás porque ahí siguen ahí siguen gobernando prácticamente todas las instituciones intocables

parlamentario o no parlamentario siempre encuentran algún amigo dispuesto

esto de que el problema lo tiene el partido nacionalista vasco y lo tiene dentro no lo tenemos todos los demás que pasan cosas siguen pasando cosas y aquí hay una impunidad absoluta

alos grupos políticos que pedimos explicaciones por la gestión que se ha realizado en esta sociedad del dinero público por lo tanto el problema lo tenemos nosotros ya digo son datos

el dinero destinado a publicidad y propaganda lo que se ha dedicado a viajar durante todos estos años trescientos setenta y cinco mil euros

etcétera etcétera etcétera y puesto que tenemos todos esos datos la conclusión a la que llegamos es que esta sociedad evidentemente disolverla ustedes han presentado una transaccional que reconoce de alguna forma que esta sociedad no ha sido y por eso proponen todo lo que proponen aplicar racionalidad y austeridad en los gastos establecer mecanismos que permitan una dación de cuentas etcétera etcétera y los años anteriores qué se hizo nada pero en todo caso yo le preguntaba antes cuántas empresas de este tipo existen en euskadi cuántas personas tienen ustedes colocadas

de la sopa boba yo les hacía esta pregunta les hacía una pregunta para ver si en algún momento

responder cuánto nos han robado ustedes a los ciudadanos vascos cuánto nos siguen robando a día de hoy y cuánto sobre todo vamos a permitir que nos sigan robando en el futuro a través de estos mecanismos para colocar a su gente con

algún día habrá que contestar a esa pregunta en todo caso nosotros seguiremos haciéndolas

muestra su profunda preocupación por la ruptura del alto al fuego en vigor desde mil novecientos noventa y cuatro

y expresa su dolor por las víctimas que dicho ataque ha causado partes en conflicto valora positivamente la

anunciaron el cinco de abril de dos mil dieciséis y confía en que

solicita que se desbloquee el mecanismo internacional de detección de violaciones de alto al fuego propuesto repentinamente por los

rechaza la utilización de la fuerza para la resolución de cualquier conflicto territorial que han de ser resueltos mediante el diálogo y el respeto a la voluntad mayoritaria de las poblaciones afectadas que deberá expresarse de forma democrática y sin coacciones de ningún tipo dei egiten die